gracias presidenta bueno yo me voy a centrar en el núcleo de la cuestión

proposición no de ley no sé qué opina del aforamiento de los cargos públicos

como que es que la audiencia nacional es un tribunal ordinario

se juzgan allí todos los terroristas se juzgan allí y por lo tanto no es un tribunal excepcional eso yo creo que ya está resuelto exactamente igual que la ley de partidos que está avalada por

tribunal de derechos humanos de estrasburgo y efectivamente tiene usted razón señor

que tienen los cargos públicos concretamente vamos a hablar de los políticos que

que ser la enjundia de la cuestión cuáles son las garantías y en las garantías son como usted bien ha dicho inviolabilidad inmunidad y

es simplemente un tema puramente procesal penal y concretamente supone única y exclusivamente una alteración de las reglas de la competencia objetiva

los aforados son enjuiciados en todo caso no por el tribunal

por el tribunal que corresponda si no por órganos de distinta categoría en este caso superior

también está la inviolabilidad una garantía o un privilegio que diría usted que tenemos todos los cargos públicos entraremos en eso en principio en principio

la voluntad de la que parte esta iniciativa suya pero entendiéndola y compartiéndola yo creo que la ha podido esta vez también pues el voluntarismo y este discurso un poquito fácil

pero en realidad digo esto porque fundamentalmente no podemos

sabiendo cuál tiene que ser el final porque para entonces para eso no necesitamos para este viaje tantas alforjas quiero decir

que antes de eliminar lo que es posiblemente lo que pueda ocurrir o suprimirlos o reestructurarlos hay que debatirlo

y yo creo que en eso también podíamos estar de acuerdo y hay que ver cuáles son todas las opciones

sobre la aplicación de la justicia en nuestro país que también toca vale también para la articulación territorial vale para el blindaje de los derechos

el de la jefatura del estado y todo esto se llama reforma de la constitución

y esa reforma se debe plantear de verdad y sin más demora

pedagogía que no demagogia y que como dice una amiga mía acaban igual pero

porque además cómo podemos hablar de eliminar

poniéndonos puros señor poniéndonos puros y como

y son las herramientas del sistema que nos diferencia del resto de los ciudadanos por ser cargos públicos las dos nos diferencian del resto de los ciudadanos

de acción política va a tener inmediatamente una acusación penal una querella en fin y va a responder ante los tribunales afortunadamente y cuando un ciudadano imputa delitos a otros

ahora bien cuando un parlamentario como se ha dado en esta sala justifica por ejemplo

de muchísimas familias no solamente no es juzgado en instancias ordinarias si no que además va a conseguir que este denostado tribunal supremo que tenemos

delictivas están bajo protección absoluta de la inviolabilidad y cuando un parlamentario fuera

atribuye delitos de colaboración con el terrorismo a otros miembros de esta cámara tampoco es encausado

la misma condición es decir por su condición de aforado

que más denostan lo que llaman privilegios son casualmente los que más los utilizan

siempre somos esclavos de nuestras palabras señor maneiro siempre por lo tanto hay que tener mucho cuidado porque el aforamiento y la inviolabilidad son un problema posiblemente o no lo que es un problema es la impunidad pero no vamos a discutir que se vulnera el principio de igualdad cuando nos juzgan en determinadas instancias diferentes

se vulnera el principio de igualdad cuando nosotros décimos lo que nos da la gana amparados por nuestra inviolabilidad los ciudadanos tienen derecho el resto de los ciudadanos tienen derecho a hacer lo mismo

o lo son todo o en definitiva son solamente garantías que es de lo que se trata de discutir

el principio de igualdad que nos juzgue otro tribunal probablemente vulnera el principio de igualdad que no tengamos esa segunda instancia a la que usted dice

vulnera el principio de igualdad nuestra inviolabilidad por lo que manifestamos votamos etcétera como le digo en el ejercicio de nuestra labor política seguramente también porque el resto de los mortales

miren ustedes qué casualidad sin entrar en terrenos que para cualquier otro ciudadano va a ser

se puede perfectamente hacer política con respeto se puede mantener las discrepancias con educación y se pueden mantener confrontaciones política sin que esto un foro parlamentario parezca a veces la barraca del maño que es lo que parece o sea que nosotros

defendemos única y exclusivamente que los políticos nos dediquemos a la política no estar permanentemente en cualquier tribunal ante cualquier denuncia

bien sea por un asunto de cohecho impropio

judiciales del tribunal realmente del sitio donde están las

especial defendemos poder realizar la tarea para la que nos eligen

cuando nos dejan de elegir seguir siendo igual que el resto de los ciudadanos y defendemos revisar el sistema no desmantelarlo

sin tener ningún tipo de estudio previo sin analizar las cosas en profundidad y sin saber exactamente qué es lo que queremos porque lo que no se puede querer es una caso y la contraria es decir

porque esto sí vulnera el principio de igualdad pero esto no vulnera el principio de igualdad y claro el principio de igualdad lo que tiene es que se vulnera o no no es a veces sí y a veces no

en esa posible enmienda transaccional es revisar el sistema y dejarnos de demagogias y decir estas cosas bonitas que parecen toca revisar el sistema toca revisar el sistema

el sistema de garantías que es cómo hay que llamar las cosas

garantías porque para definir o prerrogativa o privilegio o garantía hay para todos los gustos porque de la misma manera que usted ha encontrado a millónes de juristas y a millónes de miembros de la universidad del ámbito académico que puedan estar en contra del aforamiento los hay a patadas que están a favor

como todo y por lo tanto lo que toca lo que toca es adecuar y en su caso reformar esas

y posiblemente nos llevemos una sorpresa porque de la misma manera que pueden desaparecer

puede ocurrir que igual quien tanto denosta ahora esto

esa posibilidad de decir lo que le de gana en determinados foros

de limitar ese llamémosle privilegio por tanto lo que nosotros dejamos meridianamente claro en esta enmienda y que obviamente puede ser

en ese sentido es decir en el sentido de abrir y estudiar sin más demora inmediatamente dentro de una reforma constitucional dentro de lo que sea esa posibilidad de adecuar nuestro régimen de garantías

de las personas con garantías porque esto del foro también del aforamiento en fin para otras cosas no hay tanto problema quiero decir algunos fueros no se tocan otros sí

es cuestión también en fin de ser serios vamos a ver vamos a ponernos y esa es la transaccional que yo propongo y que creo que puede votar cualquiera de los miembros de esta cámara

señores consejeros señorías nos encontramos ante un debate ciertamente interesante señor maneiro

de los análisis de las decisiones que va a haber que tomar en breve y que es un debate abierto

hasta que no se resuelva es cierto también que esta iniciativa que usted nos presenta ya ha sido sustanciada y debatida en el congreso de los diputados no lo digo como algo negativo lo digo para contextualizar

esta iniciativa es un corte y pega de la moción que ustedes tuvieron oportunidad

rechazada en un momento político y social como en el que nos encontramos

hablar de supresión de privilegios tiene entre otras cosas además de lógica

una indudable aceptación ciudadana en términos generales

y también política por eso es muy importante que diferenciemos que hagamos un esfuerzo de sensatez para diferenciar la oportunidad

para empezar que expliquemos bien las cosas que centremos el debate en sus justos términos

sino que tienen una profunda naturaleza jurídica

la demagogia porque alguien podría tener interés en estos momentos oscuros en aportar más oscuridad en lugar de más claridad

en enmarañar el discurso confundir a los ciudadanos en lugar de aportar rigor seriedad que es la que debería de ser inherente al ejercicio de la política bien entendida esto todo sea dicho de paso sin referirme

de lo que estamos sentados en esta cámara en todo momento

tenemos entre otras también la obligación de esto que se ha venido a definir como la ejemplaridad

estamos todos a veces acertamos en otras ocasiones nos equivocamos somos políticos pero a la vez somos seres humanos aunque a veces no lo parezca podemos cometer errores pero es cierto que en este preciso momento en el que hay muchos ciudadanos que están reclamando que pasen cosas que hay muchos ciudadanos que están sufriendo determinadas circunstancias muy complejas somos los representantes políticos los que además de acertar con nuestras decisiones

determinados debates e intentar ser rigurosos cuando se abordan por eso la democracia también es claridad claridad de conceptos claridad de las reglas del juego claridad de los propósitos claridad de los compromisos claridad de los cálculos

en los medios por eso me gustaría comenzar dejando o compartiendo con ustedes algo que a mi juicio no admite duda

hablando de prerrogativas no estamos hablando de privilegios no estamos hablando de privilegios en la función representativa que probablemente existan algunos privilegios

algunas de las circunstancias que rodean el estatus de determinados políticos o funcionarios públicos pero sobre lo que estamos hablando ahora es sobre

nada que ver con el concepto de privilegio se ha hablado también aquí procesal más moderna en ningún caso considera el aforamiento esto es un hecho objetivo como un privilegio de carácter personal

son considerados fundamentalmente especialidades funcionales prerrogativas procesales eso es lo que realmente son que tienen su naturaleza jurídica y por lo tanto también en este caso política

y el funcionamiento de la institución de la que forma parte el aforado es decir permitir el ejercicio pleno de sus funciones esa es la naturaleza jurídica no solo en españa sino en el hecho comparado

de inviolabilidad se ha hablado de inmunidad y se ha hablado de aforamiento y se ha apuntado cuál es el contenido el jurídico

no voy a abundar en ellos pero sí me interesa en este caso concreto el aforamiento

y el ejercicio de las funciones constitucionales relevantes eso es el aforamiento

del que también contamos en esta cámara dicho de otra forma se pretende proteger

tanto del órgano legislativo tanto de esta cámara como del jurisdiccional

injerencias o presiones que pudieran existir dicho de otra manera poco rigurosa probablemente el aforamiento es de ida y vuelta protege a esta cámara

fortalecer la independencia del juzgador y en ese sentido el tribunal constitucional ha tenido múltiples ocasiones de pronunciarse y siempre que lo ha hecho

el aforamiento como privilegio de los parlamentarios hay innumerables sentencias del tribunal constitucional pero

una del año mil novecientos ochenta y cinco a mí me parece de las que he tenido oportunidad de conocer quizás la más gráfica porque dice expresamente que el aforamiento no puede concebirse como un derecho personal del que goza el parlamentario en su condición de miembro de una cámara legislativa

algo a este debate pretende proteger a los legítimos representantes del pueblo de acciones penales

de opinión esto sería la inviolabilidad porque hace mención expresa en la sentencia

o políticas que entre otras hipótesis confunden a través de la utilización inadecuada de los procesos judiciales los planos de la responsabilidad política y la penal cuya delimitación es uno de los mayores logros del estado constitucional como forma de organización

o finalmente proteger la independencia del órgano y el ejercicio de las funciones del cargo constitucionalmente relevantes refiriéndose expresamente al aforamiento

no es en beneficio del aforado es en beneficio de la institución y que muchas veces es una reducción de sus propios derechos

y paradójicamente porque el aforamiento lo que también es limita un derecho constitucional a un recurso a una segunda instancia del tribunal supremo y esto es algo que no se suele decir y conviene también que lo digamos y conviene también que se comparta porque ayuda a tener un debate más objetivo más certero y por lo tanto a intentar encontrar las mejores soluciones y es verdad que en españa

porque existe un aforamiento de naturaleza y de carácter político

a la hora de remitir el tratamiento el hecho procesal de determinados personalidades de carácter funcionarial o público se da en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se da en los miembros de las fuerzas armadas

de jueces de fiscales es decir el aforamiento presenta también varias caras y varias circunstancias en fin

creemos que es una figura que ha sido útil que ha garantizado y que garantiza y que protege el libre ejercicio de la actividad política y que protege ese ejercicio

nadie está hablando de que a un político no se le juzgue sino que se le juzgue en determinadas circunstancias y por un tribunal que por su carácter colegiado probablemente tenga más capacidad de evadir presiones de determinadas presiones pero lo que quiero decir señor maneiro son dos cosas la primera de ellas es que estamos dispuestos a este debate nos parece

también se someta a reflexión estas figuras pero creemos que hay que hacerlo con mucha delicadeza no delicadeza

para no generar o abundar en una sensación

somos unos seres privilegiados sino que estas figuras cuya naturaleza era como le digo preservar y garantizar

de la actividad política solo las modificaciones que se hagan señor maneiro solo contribuyen a seguir mejorándolo no contribuirán a engordar determinadas leyendas determinados mitos

respuestas urgentes a reivindicaciones de enfado y creo que si lo hacemos así y no a golpe de proposiciones no de ley que cierran probablemente por la contundencia

seguro que estaremos aportando algo muy interesante para fortalecer para mejorar nuestro sistema
amaitzen joan sémper jauna en el procedimiento democrático y también la imagen que tienen los ciudadanos de nosotros muchas gracias señora presidenta eskerrik asko sémper jauna

sí muchas gracias yo he querido hacer un debate serio y riguroso y yo he hecho todo el esfuerzo posible y así está presentada nuestra iniciativa original un esfuerzo

lo que es el aforamiento de lo que es la inviolabilidad o de lo que es la inmunidad creo que he sido riguroso y no he tratado de confundir a nadie tampoco he hecho populismo demagogia ni he tratado de engañar a nadie he planteado un asunto que ahora mismo está en la calle que preocupa a los ciudadanos y he planteado una iniciativa a partir de la cual podrían darse

para ir hacia lo que nosotros consideramos que es indispensable la supresión de todos los privilegios existentes ustedes en concreto consideran que esto del aforamiento no es un privilegio en fin nosotros pensamos que sí pero en todo caso podría haber sido quizá posible llegar a alguna enmienda de transacción para dar pasos en ese sentido puesto que

a la discusión y a hablar de este asunto aunque finalmente no van a votar a favor de esta iniciativa

y ahora aquí y en otras instituciones porque nos parece que es un asunto relevante y que se trata de hacer algún tipo de presión para que algunas cosas

es cierto que los aforados no tienen derecho a la segunda instancia

y lo ha dicho el señor sémper pero es que yo también lo he dicho y está escrito en la iniciativa no he tratado de engañar a nadie

esta institución habría que suprimir porque efectivamente pensamos que es un privilegio pero es que en algún caso concreto incluso podría resultar perjudicial para el aforado que no tendría derecho a la segunda instancia

haya hecho ningún tipo de totum revolotum ni cosa parecida efectivamente he señalado que hay más

políticos y todavía habría más efectivamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado o los militares

si quieren ustedes que nos centremos en los cargos políticos podemos centrarnos en los cargos políticos y llegar a algún tipo de transacción en ese sentido o incluso podemos también comparar el número de aforados políticos con el número de aforados políticos existentes fuera de españa en otros países europeos en otros países

puede considerarse razonable que existan tantos aforados en españa evidentemente no es cuestión solo de cantidad señora mintegi sino de calidad digo y décimos en la iniciativa que hay muchos pero también digo que no debería haber

pensamos que no debería haber ninguno

la señora gallastegui me decía que entiende y que comparte la iniciativa planteada en fin

aunque por otro lado llama a la reflexión y nosotros estamos dispuestos a reflexionar y sabemos que esta iniciativa supondría

reformas constitucionales por qué no podemos decir desde esta cámara también o pedir al gobierno de españa que se plantee la posibilidad lógicamente no de reformar la constitución solamente para esto pero plantear la posibilidad de que una vez que se vaya a abrir el debate sobre la reforma constitucional también se incluya este asunto decir ya

que esta cámara pueda decir que efectivamente esos pasos podrían empezar a darse o al menos tenerlos en cuenta una vez que se inicie la reforma constitucional yo he tratado de distinguir también la inviolabilidad de la inmunidad

en el aforamiento decía la señora gallastegui que el problema principal es la impunidad y estoy de acuerdo y creo que se está más cerca de la impunidad

cargos públicos en concreto les juzga el tribunal supremo o el tribunal superior de justicia

son tribunales más politizados y por lo tanto estamos más cerca de la impunidad y en todo caso es evidente que el aforamiento retrasa el procedimiento y provoca

y que trata a determinados ciudadanos de modo distinto a como se trata a otros ciudadanos y nosotros pensamos que esto es una desigualdad si ustedes no consideran un privilegio

con esta diferenciación de trato que en el día de hoy no tiene ningún sentido no queremos por lo tanto desmantelar nada en fin se trata de adecuar

la señora gallastegui todo lo que haya que reformar para acabar con estos anacronismos ya digo el señor sémper hablaba de debate interesante y abierto pero de intentar hacer un esfuerzo de sensatez frente al oportunismo

ni demagogia ni populismo he explicado perfectamente la cuestión he tratado de distinguir la inviolabilidad de la inmunidad del aforamiento

serían los pasos para acabar con esta desigualdad de trato

delicado pero no veo otra forma plantear este debate que a través de una proposición no de ley

que nuestra propuesta es que no haya ninguno y que para eso evidentemente las reformas que hay que hacer son muy profundas habría que reformar la constitución española
maneiro jauna amaitzen joan habría que reformar el estatuto de gernika y habría que llevar a cabo

pero que creo que en todo caso son posibles hacerlas no ya mañana pero sí en los próximos meses o en los próximos años y no estaría mal que esta cámara

y dijera claramente que todos los ciudadanos somos iguales que no queremos ninguna protección especial y que no queremos ningún privilegio

y realmente es una pena que no se haya acercado tampoco a poder hacer algún tipo de enmienda transaccional juntos porque

en algunos puntos coincidimos con lo que ha dicho ella realmente

gallastegui como la señora otadui también creemos que no es un privilegio una garantía una garantía que no debiera ser necesaria en el caso de que cualquier ciudadana o cualquier ciudadano

de sus opiniones en base a una sociedad demócrata que respeta la libertad de expresión pero no ocurre y de hecho

precisamente de que este aforamiento ha sido una suerte de barrera o de protección

y que han provocado que se nos abrieran diligencias

en año y medio no sé si han sido dos o tres veces guk

que buscamos nuestro objetivo es la suspensión de todos los privilegios existentes hain zuzen ere

pero como cuando hay intervenciones de este tipo y cuando hay iniciativas de este tipo siempre surgen cosas de manera tangencial hay algunas cosas que sí quería contestar yo

es que las garantías que tenemos todas las garantías que tenemos por qué tienen que desaparecer unas y por qué no otras

usted al final lo que viene a decir es que no haydelitos de opinión y sí hay delitos de opinión

ni decentes que esa es otra cuestión hay algunas opiniones que son delito porque por eso sí está tipificado en el código penal y nadie ha puesto en cuestión que

imputaciones inexactas todas esas cosas que se hacen muchas veces o esos llamamientos

a muchas cosas que no quiero poner yo dar más detalles existen los delitos de opinión

son no solamente decentes sino legales no todas no todas y por eso existen

yo puedo pensar que usted es una persona estupenda o no pero según lo que opine y lo diga puedo estar ofendiendo

y eso es un delito de opinión o sea que vamos a ir con cuidadín

fundamentaciones por la que usted cree que los aforados tienen que dejar de serlo es porque

o incluso esos que también vamos a ver presumimos la mayoría de edad de los tribunales solo de los juzgados de instrucción de las audiencias provinciales no vamos a presumir la mayoría de edad de los tribunales

de ellos porque claro si formamos parte de manera quiero decir porque la mayoría de edad

qué es un tribunal ya es independiente o no lo es depende quiero decir o lo son o no lo son y la independencia de los jueces sea cual sea otra cosa es que yo esté de acuerdo con usted

no tenga que ver ningún tipo de nombramiento de carácter político

pero los jueces de instrucción no tienen ideas políticas no tienen pensamiento simplemente se dedican a juzgar oiga claro que sí

derivado de un accidente de tráfico porque se le ha muerto un hijo pues tendrá una posición distinta que otro a la hora

y lo único que quiero decir es que el grupo socialista no va a votar a favor de la enmienda o sea de la proposición

sí muy brevemente señora presidenta lo que me parece que estamos en un punto

porque además abrir de esa manera

maneiro hablando de lo politizados de determinados tribunales es verdad que nos lleva

no nos lleva a ningún sitio porque la casuística puede ser tan amplia

pero en todo caso esa no es la naturaleza al aforamiento señor maneiro usted ha dicho una cosa que yo comparto plenamente

no queremos una protección especial y no queremos ningún privilegio

pero vamos nosotros también en un momento como el actual y si me lo permiten a poner un poco también en valor el ejercicio de la política

si preguntáramos en la calle al ciudadano medio

las inmediaciones del parlamento seguro que sacaría una relación

de los privilegios absolutamente injustificados absolutamente vergonzosos y vergonzantes de los que disfrutamos quienes estamos aquí sentados

yo he discutido con amigos míos sobre el hecho de que tenemos por ejemplo una compensación en nuestra pensión hasta llegar al cien por ciento por ejemplo

de que tenemos paro de que tenemos una serie de privilegios

por eso le decía señor maneiro que creo que

pero también contando las cosas como son y vincular aforamiento con privilegio es un profundo porque no es un privilegio se podrá estar de acuerdo o no se podrá defender que es una figura que ya no tiene sentido

desde múltiples puntos de vista que el aforamiento siga siendo una figura que exista o que desaparezca pero no se puede vincular con privilegio

jurídica y política como privilegio porque todos los suplicatorios que se ha solicitado últimamente estoy hablando del congreso

se han concedido porque no supone que a alguien se le deja de juzgar se supone que se protege insisto a la institución en la que está representado también porque

de lo penal ante un juzgado de instrucción puede tener

que vaya encaminada a perjudicar a alguien por sus manifestaciones políticas y esto nos debe llevar a la reflexión señor maneiro tenemos que encontrar ese equilibrio

las medidas que protejan el ejercicio de la política que por lo tanto protejan

pero sin incurrir obviamente en ninguna clase de privilegio

porque creemos que puede haber una actualización también de estos conceptos

ya en seis meses y es un privilegio con esos mimbres no porque quizás usted puede tener otra intencionalidad legítima de carácter netamente político y eso

todos pero flaco favor estaríamos haciendo si jugáramos todos a eso muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

moratoria bat eskatu nahi dizuegu como decía venimos nuevamente con este debate al parlamento y es cierto que este debate es recurrente ayer mismo y esta vez no por responsabilidad de eh bildu tuvimos ocasión de volver a debatir sobre el tren de

queremos pedir o queremos poner el foco en una de las realidades que se han conocido sobre el proyecto del tren de alta velocidad una realidad muy preocupante diríamos nosotros y nosotras y también hacer una propuesta es decir no solo

en la denuncia que nos parece necesaria que nos parece imprescindible diría todavía más para garantizar la eficacia de la gestión de lo público y para garantizar la transparencia en como se ha dicho en esta cámara y en muchísimas ocasiones el proyecto

al menos el más costoso en eso sí estaremos todos y todas de acuerdo que jamás haya acometido esta administración la administración de los tres herrialdes de la comunidad autónoma vasca no le ocultamos tampoco a nadie que para nosotros el tren de alta velocidad es el ejemplo

y probablemente por su magnitud más perverso de un modelo de trasvase de capital público a manos privadas esa mal llamada colaboración público privada

una cierta lógica en la declinación esconde siempre el enriquecimiento sistemático de unas grandes empresas que nada tiene que ver por tanto con el emprendizaje

sino que tiene que ver directamente con seguir potenciando con dinero público con el sacrificio de todos y todas y también de nuestro medio natural para enriquecer

casualidad también será porque este país es pequeño suelen tener también grandes amigos que también se preocupan de que esas grandes empresas sigan siendo grandes y sigan participando de los grandes proyectos

y nosotros creemos que ese es un foco al que jamás se le debe perder atención porque en esta cámara se ha hablado en más de una ocasión de un proyecto que va a costar más de diez mil millónes de euros si uno atiende

no parece descabellado afirmar lo que hoy estoy afirmando en esta tribuna que pueda llegar a costar más de diez mil millónes de euros se trataría simplemente de aplicar el porcentaje de sobrecoste que se ha hasta ahora en lo realizado a lo que queda por realizar que es más de la mitad ayer la consejera señalaba

la respuesta del gobierno central seguía siendo nula más o menos

que no estaba usted diciendo la verdad porque parece que en no sé qué boe del siete u ocho de mayo no recuerdo muy bien la fecha

que hacía alusión a los ciento treinta y uno millónes famosos para nosotros

hay una lógica que no entendemos señora consejera y sabemos que hoy no es una interpelación pero permítame que la diga aquí porque bueno representantes del partido nacionalista vasco intervendrán luego y quizá ellos

si el tramo al que usted hacía alusión como un tramo necesario en ejecución y que no se estaba llevando a cabo es un tramo que se va a ejecutar por adif y adif está siendo investigada por presunta malversación de fondos públicos y por compra de funcionarios

no le parece un tanto irresponsable pedir que a esa misma empresa que a esa misma entidad en este caso institución que es adif se le

la aceleración en la ejecución de ese tramo

que oye en su entorno que alguien está siendo imputado o es imputado incluso ha sido detenido por no sé qué asunto tan turbio como este

existiría un cierto aire de premura un cierto aire de no sé si sentido común o no porque suele ser el menos común de los sentidos pero por lo menos de prudencia y esa sí existiría sin embargo aquí nos da igual que

haya estado implicada con adif en una parece que

pero hacerlo rápido por eso le decía antes que pese a la insistencia

la realidad es que en la gestión del dinero público para con los grandes proyectos

aquí probablemente no podamos y mejor echarle en cara a nadie que hay un aeropuerto sin aviones muchos aeropuertos hay de una cierta desconexión

el aeropuerto de castellón bien pero tenemos una macroinfraestructura en la que seguimos inyectando dinero y dinero pese a los indicios cada vez más razonables de irregularidades ya

tenemos también la ejecución de un tramo que a sabiendas de que no va a ser utilizado se sigue pagando y se sigue ejecutando probablemente para que la constructora no pierda dinero pero aceptando de facto que quienes tenemos que perder dinero somos los ciudadanos y ciudadanas un sentido de lógica y de mesura en la aplicación en el ejercicio público nosotros con esta proposición no de ley lo que pedimos es transparencia fundamentalmente y sobre todo transparencia y pedimos que se paralicen las obras que se haga una moratoria que se analice al detalle el por qué

que de manera reiterada y hoy mismo ha vuelto a señalar que las irregularidad que se vienen cometiendo en la adjudicación de los tramos del tren de alta velocidad y en toda

cada vez que comparece el tribunal vasco de cuentas públicas señalamos las irregularidades

tenemos un debate en torno a si el nivel de la irregularidad es mayor o menor más o menos grave hay quien dice que esas irregularidades tienen que subsanarse pero las irregularidad

tampoco eso parece un ejercicio muy eficaz muy práctico de lo público porque parece que tampoco sabemos o no queremos o no podemos

corregir las irregularidad que el propio tribunal vasco de cuentas públicas año tras año y le insisto hoy también con el del dos mil doce vuelve a señalar

los proyectos antes de ejecutarse se planean y cuando se planean se analizan los costes y cuando se analizan los costes se analizan los costes en función de los materiales que se van a emplear de un hipotético alza de los precios en esos materiales ese es el sobre coste lógico y también

y el proceso de coste será mayor o menor todo eso

entendemos que en este caso también se habrá seguido esa lógica no tenemos porqué pensar que no se haya hecho así pero si se ha seguido esa lógica y los sobre costes son los que son

del sobre coste lógico del alza de los precios dónde está la responsabilidad a mí me parecería de todo punto irresponsable que quien no es capaz de planear con eficacia

de manera sistemática y reiterada siga haciéndolo y me parece que ahí este gobierno tendrá alguna responsabilidad yo no le imputo ni mi grupo le imputa a

la responsabilidad de todo lo que pueda estar apareciendo en el tren de alta velocidad ya sea

ya sean los sobrecostes ya sea incluso

no lo hacemos lo que sí que le décimos lo que sí que le pedimos y casi le instamos es a que si conoce

irregularidades que tal vez no sean ilícitas o tal vez sí pero en cualquier caso no demuestran una buena gestión de lo público

hace seis meses no había nada el proyecto era maravilloso se estaba ejecutando bien

una banda de cavernícolas que querían retornar a euskal herria al primitivismo más rural y ancestral y que se oponían al tren de alta velocidad por eso esa era la foto en la que nos hemos manejado durante años y a los que a nosotros nos tocaba el papel de trogloditas dicho

sin embargo en los últimos meses hemos sido conociendo con cada vez más precisión cómo

de cuentas públicas señalaba irregularidades sostenidas cómo

el seguimiento y observancia a las condiciones de seguridad y salud laboral se hacían

saltos sobre la misma no preservándola no respetándola hasta ocasionar fallecimientos en el tajo en el puesto de trabajo hemos visto cómo se manipulaban explosivos

ni tutela para lo mismo hemos conocido cómo se han vertido a ríos

desde luego calificada de residuo y lo hemos ido conociendo y se nos ha dicho que se iba a subsanar junto a eso

nosotros le décimos con sinceridad si hay irregularidades pónganse encima de la mesa señálense

porque si este gabinete no tiene la responsabilidad en muchas de las irregularidades que puedan salir sí tiene una responsabilidad para con los ciudadanos y ciudadanas que es la de la transparencia

o como se decía antes ahora ya no se puede decir tanto después de lo de bárcenas pero son bolsillos de cristal esto de la gestión de lo público

la realidad o esa es la petición que nosotros le trasladamos con las dos cuestiones le pedimos una paralización que si lo prefiere podemos llamar moratoria para que haya un análisis severo y riguroso sobre cómo se está gastando nuestro dinero y remarco nuestro dinero para que se vea si

y a partir de ahí se pueden subsanar o corregir las deficiencias y en todo caso para que haya un debate social interprete cuáles son las necesidades reales de este país por encima de las necesidades reales de cuatro constructoras que les está saliendo muy rentable el tren de alta velocidad seamos o no seamos una isla ayer usted señora consejera decía que ahora éramos una isla que en el futuro en un futuro así imperfecto un futuro declarativo puede ser mañana o dentro de cincuenta años podríamos no ser una isla lo que sí es cierto

hay una mansión y esa mansión es la de los constructores porque a ellos les da igual porque el trazado va a estar sirva o no sirva pero eso no es tampoco una gestión eficaz

y esta sí que nos parece más lógica por un mero sentido de prudencia con independencia del parecer

es que no se siga contratando con una empresa y con una institución

por una lógica de actuación tan poco legítima

poco edificante y tan contraria a lo que se ha debatido en el punto anterior como el enriquecimiento con el dinero de todos a través de una financiación irregular y de la compra de voluntades de funcionarios públicos

que haya un debate social y que en ese debate social podamos prefijar una vez conocida toda la información y para eso necesitamos el concurso y la colaboración de todos

qué es lo que este país necesita que es lo que este país demanda y qué es lo que de verdad da respuesta a las necesidades presentes no las futuras sino sobre todo las presentes para poder planificar un futuro donde todas las personas

iba a decir que me da la sensación pero creo que es mejor decir que es bastante evidente que eh bildu en fin digamos que quiere aprovechar un caso puntual de presunta corrupción en las obras del ave en cataluña totalmente censurable evidentemente que está en fase de investigación para

en euskadi y a mí efectivamente esto me parece muy forzado y me parece un exceso que en fin nos parece absolutamente inaceptable conocemos los hechos parece ser que técnicos de adif y determinados dirigentes de una determinada empresa parece que habrían amañado presuntamente el concurso de algún tramo del ave en cataluña y luego además habrían engordado los costos para embolsarse unos seis millónes y efectivamente están acusados de malversación de fondos públicos cohecho y falsedad documental y este hecho es ciertamente grave ciertamente preocupante y obviamente hay que seguir investigándolo y lo que también nosotros queremos pedir desde aquí que este hecho se investigue hasta el final para que los responsables

de corrupción con determinadas adjudicaciones y determinados trabajos que alguna empresa ha venido realizando o van a realizar

pone el foco en determinados tramos cita algunos hechos que han ocurrido

se agarran a unas presuntas irregularidades técnicas detectadas por el tribunal vasco de cuentas públicas

que se hace regular o que es claramente mejorable para

y en esta empresa en concreto lo que decía el tribunal vasco de cuentas públicas y está recogido en los medios de comunicación y en esta iniciativa es que hay excesivos juicios de valor en las propuestas de adjudicación de estas obras públicas dando excesivo valor a las opiniones

en transparencia para que casos como el conocido en cataluña pues no puedan ocurrir en euskadi efectivamente hay que intentar que haya la máxima transparencia posible

de corrupción o de cosa parecida malversación de fondos públicos etcétera etcétera etcétera pero unir una cosa con la otra

del tren de alta velocidad en euskadi nos parece ciertamente un exceso que está absolutamente fuera de lugar

que hay un proceso judicial en marcha y que nosotros como gobierno seguiremos trabajando con la mayor pulcritud en todo lo que son las adjudicaciones y el seguimiento de las obras esto es lo que nosotros pedimos al gobierno que trabaje

pulcritud y que se haga un seguimiento absolutamente riguroso de las obras esto es lo que queremos que se haga en el futuro y de ahí

un proceso judicial en marcha tiene que investigarse

con la máxima pulcritud en todo lo que son las adjudicaciones y ya digo que de ahí nuestra enmienda de tres puntos por un lado para que este parlamento

que ya en otras ocasiones ha dicho es decir que defiende el tren de alta velocidad como infraestructura necesaria para la mejora de las comunicaciones entre euskadi y el resto de españa

que estas obras tengan que acelerarse ni cosa parecida porque efectivamente nosotros pensamos que estas obras aun siendo necesarias pues seguramente no son a día de hoy prioritarias lo prioritario a día de hoy es garantizar la mejor educación pública posible la mejor sanidad pública posible y

estas obras del tren de alta velocidad en euskadi no se pueden paralizar tienen que continuar al ritmo que se considere necesario no pensamos que haya una urgencia

no vamos a instar a ningún gobierno nunca lo hemos hecho a acelerar las obras no eso no pero sí que décimos que estas obras tienen que acabarse evidentemente cualquier otra propuesta nos parecería un disparate a través de esta enmienda también instamos al gobierno vasco y al gobierno español a reforzar los controles de las obras públicas

cualquier posibilidad de desvío y de fraude en su ejecución por parte de los concesionarios evidentemente se trata de hacer un uso riguroso del dinero

no vamos a instar a ningún gobierno a paralizar estas obras por lo que ha ocurrido en otros lugares y finalmente un tercer punto que también en otros debates

al gobierno de españa a impulsar las actuaciones que aseguren el cumplimiento de los criterios y prioridades establecidos por la unión europea en materia de infraestructuras ferroviarias de alta velocidad y además a corregir los planes inconexos y caprichosos de la red de alta velocidad llevamos tiempo denunciando porque es una obviedad que especialmente en el resto de españa pues se han hecho las cosas rematadamente mal ha habido excesivo gasto y se han priorizado determinados tramos únicamente para beneficiar los intereses de algunos políticos esta es la enmienda que nosotros hemos presentado quiero decir que no estamos

y abandonar las obras del tren de alta velocidad en euskadi ni tampoco con los que durante largos años han derrochado dinero público

de españa en esta infraestructura en muchos casos por razones exclusivamente electoralistas o clientelares

ni con unos ni con otros creo que estamos en lo razonable en lo sensato

razonable y sensata como por otro lado suele ser todo lo que viene de upyd eskerrik asko maneiro jauna

gracias presidenta buenos días señorías el grupo eh bildu pide la paralización del tren de alta velocidad vasco en tanto no se resuelva la investigación iniciada en las obras del ave de barcelona

las revisiones de precios sobrecostes porque creen que ha habido un uso indebido de los fondos públicos les da lo mismo o

que las modificaciones se hayan debido a diferencias en la estructura que encarecieron lo previsto

movimientos de tierra que tuvieron por cierto señor matute un coste inferior al planeado

también les da igual que haya habido un cambio en los túneles que lo que en un principio iba a ser un falso túnel

sobrecostes injustificados acusaciones que se frene la licitación del nudo de bergara peticiones de paralización tergiversaciones

usted en esta cuestión no es creíble porque tiene una fijación

no quiere que euskadi tenga un tren de alta velocidad usted lo que quiere es que euskadi

que es lo que es ahora desde un punto de vista de comunicación ferroviaria por decirlo más suave usted demoniza

pero siempre se lo recuerdo señor matute también nosotros ahora esta vez

que usted ha declarado que los otros partidos o sea nosotros

mantienen un gran pacto de silencio lo que se puede interpretar como que se encuentran sumergido por igual en el lodazal del despilfarro y en la innumerables irregularidades

de verdad en el exceso y que carecen de un mínimo de rigurosidad y por otra parte hay una incongruencia en pedir una moratoria esto es una paralización de las obras y al mismo tiempo criticar a su juicio la inutilidad de haber finalizado

pero refiriéndome porque no voy a entrar en la cuestión de zaratamo que podríamos pero refiriéndome solo a sus declaraciones

no solo a sus declaraciones sino a lo que aparece también en la página web de su coalición que digamos de verdad que es una proclama

contra la alta velocidad vasca un conjunto de falsedades y descalificaciones que solo se corresponden con una posición numantina y totalmente fuera de todo raciocinio porque entre otras aportaciones

nula aportación financiera del gobierno de españa al ave vasco

del partido popular ha destinado en los presupuestos del doce del trece y del catorce

mil seiscientos noventa y cinco millónes de euros más los ciento treinta y tres millónes de la licitación

del nudo de bergara que se empezará a construir en septiembre

ustedes denominan nula aportación financiera

mire su petición no es ni creíble ni fiable evidentemente votaremos no a su propuesta y una vez más sufrirá una derrota

muchas gracias señora presidenta y con muchísima brevedad desde el partido socialista exigimos tolerancia cero contra la corrupción pero tampoco vamos a aceptar ni insinuaciones ni insidias

el que tenga pruebas de la comisión de un delito que acuda a los tribunales a denunciarlo y si no es valiente aquí tiene al grupo socialista que no nos temblará la mano para ir a denunciar a quien tengamos que denunciar se llame juan josé ibarretxe

a quien sea quien haya cometido un delito pero lo que no vamos a entrar es en el juego

agarrarse a cualquier excusa sin rigor ni seriedad

el tribunal vasco de cuentas públicas ha fiscalizado los contratos y las licitaciones del tren de alta velocidad y no ha detectado ninguna prueba de ningún delito señor matute la señora consejera ha salido públicamente para informar

vasca se encuentran correctamente sea un poquito más serio señor matute usted le acaba de decir al señor oyarzaba en la pnl que presentó el partido popular relativa a los ataques

de crear clima de inseguridad donde no existe eso es lo que le ha dicho usted literalmente al señor oyarzabal

crear un clima de inseguridad en el país vasco y en la licitación de las obras de del tav del país vasco donde no las hay por lo tanto

si tiene pruebas de un uso indebido de los fondos públicos en las obras del tren de alta velocidad en el paso por la comunidad autónoma vasca vaya a los tribunales y lo denuncie y si no se atreve a denunciarlo dénos las pruebas a los socialistas

una empresa que está siendo investigada por actuaciones irregulares en unas obras realizadas en cataluña

zuek proposatutakoaren aurkako izango dela observamos además en el grupo proponente una cierta desesperación señor matute porque esta misma mañana usted se ha quejado en la proposición que ha comentado el señor zaballos de acudir o de

no apoyar a las fuerzas de seguridad por parte de ustedes etcétera y

con la propuesta y usted es lo que practica en este caso señor matute

ahora inclusive recurren a informes de la guardia civil que dan por santos y buenos

porque para traer este asunto a la cámara se apoyan en las investigaciones iniciales que ha realizado como digo la guardia civil sobre supuestas irregularidades en las obras del ave madrid barcelona

trasladar unas consecuencias políticas a euskadi a esta cámara

de la cuenta de la administración general correspondiente al año dos mil once que tuvimos oportunidad de debatir hace seis meses en comisión

contratos de obras informados por el tribunal los planes de seguridad e higiene de las obras que controla ets se presentaran fuera de plazo

por la administración es posterior al acta de replanteo e inicio de las obras que es cosa bien distinta porque en ese informe ni siquiera se dice que las obras se hubiesen iniciada sin la aprobación del plan de seguridad

con posterioridad al acta de replanteo de inicio de las obras pero no hay que confundir señor matute el acta que planteó el inicio de las obras

y para ese comienzo de obras para el que se exige el plan de

y sobre ello nada dijo el presidente del tribunal en su comparecencia a preguntas precisamente mías

por cuanto el proponente establece una relación que solo existe en su imaginación entre lo ocurrido en la desviación presupuestaria de obras en barcelona y las obras que esta empresa ejecuta en euskadi no ha establecido la relación entre los sobrecostes de la obra en cataluña criticables perfectamente a tenor de las informaciones que disponemos y las actuaciones de esa empresa

en euskadi son proyectos obras y contratos que no tienen nada en común salvo la intervención parcial de esa misma empresa esta consecuencia a nuestro juicio

y tampoco es oportuna por la ocasión en que se produce no es oportuna por cuanto ya hay un cauce establecido para que el tribunal vasco de cuentas públicas emita un informe de fiscalización sobre

podido producir en las obras de ejecución que controla la administración vasca y si eh bildu quiere que el tribunal vasco de cuentas emita su informe

no tiene más que solicitarlo cuando debatamos en esta cámara el programa anual de trabajo del tribunal

una ordalía una especie de juicio de dios en el que nos propone volver a la edad media en la que cuando una personas era acusada por la inquisición debía de demostrar que era inocente ahora por orden de eh bildu es que entendamos que eusko trenbide

en unas obras por el hecho de haber contratado en su día con la empresa que está siendo investigada hoy por sus actuaciones que realizó en una obra en barcelona es culpable y por tanto debe de demostrar que es inocente que no hay actuaciones irregulares en aquellas obras en las que interviene esta empresa que está siendo investigada

pues que son consecuencia en efecto de las modificaciones de los contratos decirle también que

de debatir ampliamente sobre el asunto solamente decirle ahora

reside en los casos en que el aumento del precio va acompañado de un fraude eso es lo importante y eso hay que combatir y en esa tarea hay que ser

al desaliento y es la postura que va a fijar nuestro grupo para apoyar iniciativas

porque usted no ha aportado ningún dato que permita establecer esa relación acreditar que existen irregularidades en el entramado guipuzcoano del tren de alta velocidad

queremos decir dos cosas en primer lugar que

y lo nuevo que propone consiste en pedir que se refuercen los controles y decir que hay que reforzar supone reconocer o que no existen o que no se realizan y nosotros entendemos que ya existen controles legales suficientes

de la consejera y además propone que se posibilidad de modificación señor maneiro lo que supone anular el poder de dirección que la administración tiene en la ejecución de los contratos para llevar a buen fin los intereses públicos concernidos impide por ejemplo que la obra pueda adaptarse a la realidad de los problemas que se plantean en la construcción de los túneles porque cuando se adapte un proyecto señor matute es cierto la principal clave para controlar sobrecostes es tener un buen proyecto pero cuando se hace un proyecto no se conoce al cien por ciento la realidad de lo que hay en el subsuelo por tanto

insisto conlleven sobrecostes pero lo hay que controlar es que se realizan correctamente que no hay ningún fraude de ley

pero nunca nunca nunca porque los sobrecostes nunca dejan de producirse me parece

de tal manera que el proyecto no goza con una resistencia mayor convendrá conmigo en que esa posibilidad también existe en cualquier caso no es una propuesta que nazca de la desesperación en todo caso como señalaba la representante del partido popular

que podemos llegar a ser hasta cansinos si quiere con el tema del tren de alta velocidad también podría reconocerlo

máxime cuando representantes máximos de su partido son quienes entran al debate del tren de alta velocidad mientras que nosotros seguimos percutiendo con la misma forma y la misma intensidad luego que yo no me atrevo a decir que haya desesperación tampoco en el partido nacionalista vasco por nuestra insistencia desde luego no la veo yo en nuestra posición

yo le hablaría de lo que hice hoy de lo que hice hoy respecto al dos mil doce

respecto al dos mil diez respecto al dos mil nueve y es que las anomalías las irregularidades que detectaba se siguen manteniendo y eso sí es responsabilidad suya así como en la intervención inicial deslindar lo que puede ser responsabilidad de su gobierno del de otros anteriores en este caso las irregularidades detectadas por el tribunal vasco de cuentas públicas sí son responsabilidad suya

en la comisión de hace seis meses a la que ha hecho alusión hablaba de la necesidad de corregirlas y sin embargo hoy vuelven a existir tendremos que aceptar que es como los sobrecostes que como están por el subsuelo

por eso decíamos a la consejera que tenía una oportunidad magnífica de oro para sacar lo que hubiera bajo las alfombras no sé si hasta llegar al subsuelo pero al menos sí para sacar lo que pudiera haber

suscitando bastante interés en el propio departamento nos consta que se le está dedicando tiempo nosotros también y sabemos

no tenemos que ser los que nos guiemos por investigaciones policiales ni de la guardia civil ni de nadie nosotros estamos recopilando información y no vamos a tener ningún miedo en ir a la

nos parece que de oficio tendría que actuar la fiscalía pero que si no lo hace desde luego no tendremos ningún problema en asistir y si quiere y a lo mejor nos mandan a madrid como me mandó la consejera pero no creo yo que mi compañía en madrid le vaya a abrir más puertas de las que a usted le pueda abrir

de meter a nadie a juicio si no se lo merece usted me habla de los dirigentes de su propio partido algunos ya tienen lo que tienen

ya será la fiscalía quien tenga que citarlos y me dice que no

un clima de inseguridad donde no lo hay que yo le acusaba a él de eso y que en este caso se me podía acusar a mí bueno pues salvo que usted sepa traspasar

yo creo que algo existe yo creo que los desmanes y la mala gestión en el tren de alta velocidad se plasma en monumentos

que los pagamos usted y yo y todos y todas también existen y no es porque lo digamos nosotros es que lo dicen y en todo caso se justifican de una u otra manera pero

como digo los sobrecostes existen y no porque lo digamos nosotros es porque lo reconocen incluso intentan justificar en base a una serie de variables

parece que esa inseguridad esa preocupación ciudadana existiría por eso y para ir terminando en el minuto que me queda usted me dice señora del partido popular

ya ustedes mantienen una posición inquebrantable contra determinadas posiciones políticas en este país o contra la violencia de eta

porque tiene una fijación con ese tema verá que el argumento cae por su propio peso que como argumento dialéctico dura lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio permítame que le diga pero más allá de eso yo no sé si la oposición es excesiva o no y termino

de upyd ante un proyecto tren de alta velocidad igual sea en barcelona o sea en euskadi la alta velocidad

o una entidad y una empresa adif y corsán corviam que son las mismas que operan aquí

y no otra cosa una moratoria o una paralización de esos tramos otra cosa es nuestra posición que mantenemos y sostenemos pero lo que estamos pidiendo aquí

en esos tramos en los que participan las mismas empresas que en tramos iguales en cataluña han hecho lo que han hecho pues nos parece bastante razonable y no nos parece que tenga que significar ni siquiera defender nuestras posiciones nosotros seguimos manteniendo nuestra oposición al tren de alta velocidad pero creemos

ante el conjunto del tramo parece bastante razonable que

de caudal público se actúe con prudencia y no se siga desgastando o gastando el dinero como se está haciendo y sobre todo con ese manto de sospecha que no

no solo los medios de comunicación que alguien pueda entender cercanos a eh bildu sino

muy brevemente señor matute vamos a ver usted plantea una moratoria y nosotros

nos llevan aplicando una moratoria de hace más de veinticinco años que fue cuando se pidió que se construyera esta infraestructura llevamos veinticinco años de retraso de esta obra

con la red francesa por el norte están sin decidir también otra moratoria el retraso sistemático de las inversiones en euskadi se debieran haber hecho hace muchos años y se

por no hablar de la situación de crisis económica que seguramente esta moratoria es más potente que algunas otras

no haya ninguna irregularidad pero de ahí a criminalizar la obra pública por definición hay un buen trecho nuestro grupo

sobrecostes injustificados allá donde se procedan en cataluña o en euskadi pero el escándalo real no es que los sobrecostes

del desvío que sí lo es y por ello como digo no defendemos la postura de adif sino que el verdadero escándalo reside en la toma de decisiones sobre las líneas y lugares

escándalo en la construcción de tramos que nos son reentables lo que es escándalo es que el ramal que debe transcurrir por euskadi se halle sin construir señor matute ese es el verdadero escándalo por eso nuestro grupo

conectada con las redes europeas una nueva red ferroviaria vasca necesaria para que nuestro país pueda competir

al menos en pie de igualdad que otros territorios y finalmente

yo creo que es una cuestión que afecta a todas las administraciones con independencia del poder político y le animo a que

y sabe usted quién la adjudicó no sabe perfectamente quién la adjudicó el tripartito en la que estaban

bueno y esperaremos a ver qué es lo que ocurre en las obras que gestiona la diputación de gipuzkoa por eso digo que la obra pública tiene su particularidad y que afecta a

con independencia a su color político lo veremos próximamente señor